la oficina de la infancia y adolescencia opera como saben en el seno de la institución del ararteko

niñas y adolescentes alcanzó la cifra de quinientos veintiuno una de cada cinco de las quejas presentadas ante esta institución

a garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes recogidos en la convención de los derechos del niño

que es un tratado que forma parte por lo tanto de nuestro ordenamiento jurídico

continua siendo demasiadas veces el olvidado de las políticas públicas salvo aquellas quizá dirigidas específicamente a la infancia

y decretos tal y como viene exigido por la legislación de dos mil quince resulta esperanzador no obstante el anuncio del gobierno vasco de impulsar una estrategia de inversión en las familias y en la infancia una estrategia de carácter interinstitucional

a través de un pacto de país para la infancia y las familias que dé respuesta entre o tras cuestiones a la prevención de la pobreza infantil y a la necesidad de evitar la transmisión de la desigualdad es cierto que un acuerdo de este calado requerirá ciertamente de mucho esfuerzo y de mucho tiempo en relación con los servicios sociales para la infancia en desprotección

que en el ámbito municipal deben dar respuesta a las situaciones de riesgo

y de manera preventiva en la desprotección por último parece necesario

barra dos mil ocho regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia

que prevé la elaboración de un protocolo común de actuación en la acogida de urgencia de personas extranjeras menores de edad no acompañadas volveré más tarde sobre esta cuestión en relación con el acogimiento de los refugiados

gracias al cual se pueda dotar a nuestro sistema de la necesaria estabilidad

se han llevado a cabo importantes cambios en el proceso de admisión del alumnado con el fin de evitar el uso abusivo de los datos del padrón algo sobre lo cual el ararteko ya había incidido en la presentación de informes anuales

este ararteko no puede sino expresar su satisfacción ante la especial implicación compromiso y dedicación que en esta ocasión han demostrado los responsables educativos

al alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva intercultural dos mil dieciséis dos mil veinte

tristemente un año más debemos hacer referencia a quejas recibidas en torno a posibles casos de acoso escolar

por ello debemos valorar positivamente el establecimiento de un protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección

acoso abuso sexual infantil y de colaboración y coordinación

en la protección de los menores en relación con los estudios de formación profesional las quejas presentadas han puesto en manifiesto que existe un interés creciente

que este curso se han visto afectados por las modificaciones introducidas por la ley orgánica ocho barra dos mil trece

en lo relativo a las condiciones de acceso a los ciclos formativos de grado medio y en el apartado de becas y otras ayudas los motivos de quejas vienen a ser redundantes con respecto a los de años anteriores demoras administrativas al resolver las solicitudes

se ha consolidado como un instrumento fundamental

que residen en nuestra sociedad el equilibrio social es a nuestro juicio mayor generador de riqueza que la desigualdad social

una fuente de riqueza colectiva a la que no podemos renunciar

las voces críticas que desde distintos ámbitos se elevan contra la gestión de las prestaciones sociales

protección social en euskadi ha logrado que los índices de pobreza y exclusión sean inferiores a la media estatal y europea

en el año dos mil dieciséis ha habido un nuevo aumento del número de quejas respecto a las actuaciones de lanbide

el número de setecientos esta tendencia se confirma en lo que va del año

de quejas en este ámbito a lo largo del año dos mil dieciséis no ha habido cambios especialmente reseñables en la gestión de las prestaciones de la rgi renta de garantía de ingresos o la prestación complementaria de vivienda

uno barra dos mil quince sobre determinación de condiciones de reintegro de prestación indebidamente percibidas que es objeto de una valoración positiva

en algunas oficinas sin embargo sigue siendo muy necesario mejorar y adecuar

los titulares de las prestaciones y los miembros de la unidad de convivencia

a las necesidades de estas personas lanbide revisa con celo y exhaustividad

y perceptores de prestaciones llevando a cabo en ocasiones una interpretación estricta demasiado estricta según algunos de la normativa de aplicación

esta revisión escrupulosa de los expedientes es susceptible de provocar dilaciones en la concesión o en la reanudación de las prestaciones

de manera eficaz todavía continúa produciéndose retrasos en la tramitación de las prestaciones sobre todo en la fase de revisión y reanudación así como en los supuestos de modificación de la cuantía de las prestaciones en relación

conseguir un ajuste ágil de las prestaciones a los ingresos que declara

en este mismo sentido aunque los plazos de resolución de los recursos administrativos en general han mejorado en los casos en los que se produce una estimación de recurso este no tiene efectos inmediatos a pesar de lo recomendado por el ararteko si no que conduce a que se inicie un

el reconocimiento de la prestación hasta en ocasiones más de dieciséis meses de la fecha en que se formula la solicitud

comprobar en algunas de las quejas que tramitó el ararteko durante el periodo de referencia

parece necesario mencionar en este contexto que el ararteko ha elaborado un nuevo informe diagnóstico dos mil diecisiete que recoge el conjunto de las intervenciones de la institución

durante la pasada legislatura como conclusión de este diagnóstico

se formularon diversas recomendaciones a lanbide en fechas posteriores a la presentación a la presidenta de la cámara de este informe anual las recomendaciones formuladas recogen muchas de aquellas que provienen del examen

tramitadas el pasado año por el ararteko queda un margen importante de mejora con relación a los plazos de resolución y a la atención e información a la ciudadanía

y a la información y aclaración de los conceptos que no son objetos de procedimientos de reclamación de prestaciones

se han originado prestaciones indebidas un problema importante que afecta a un número elevado de expedientes de queja

y el impacto que la ausencia de recursos económicos tiene para estos menores por ello el ararteko

relativa a la obligada consideración del interés superior del menor en las políticas públicas y en especial en el sistema de garantía de ingresos

que afectan a menores con un grado de éxito que hasta ahora podríamos calificar

ezkurrei aurka egiteko un reto importante que la sociedad vasca tiene planteado

es la adecuada acogida de las personas solicitantes de refugio y su ulterior integración entre nosotros en este sentido nos parece clave el acceso al sistema de garantía

así como la continuidad de otros programas como son la red local de personal técnico de inmigración y el apoyo de diversos programas que favorecen la integración sensibilización social y lucha contra la

como ya he indicado antes en el caso de menores extranjeros no acompañados refugiados resulta clave el compromiso de las diputaciones forales para avanzar en un plan piloto de acogida tal y como ha demandado junto con el resto de los defensores autonómicos del estado

las personas gitanas acuden a esta institución principalmente por dificultades para disponer y mantener una vivienda para acceder a prestaciones económicas y a los servicios sociales así como para inscribirse en el padrón municipal y ser consideradas vecinas de un municipio

un deterioro urbanístico importante y requieren la puesta en marcha de procesos decididos

también suelen ser frecuentes las quejas que plantean problemas en las relaciones vecinales

se han recibido quejas sobre las dificultades administrativas que sufren las familias

de parejas lesbianas también se ha abordado la atención a la diversidad afectivo sexual y de género en el ámbito educativo

entre las instituciones con capacidad de intervención que sitúen en el centro de sus actuaciones el interés y los derechos de estos niños y niñas y adolescentes de acuerdo con lo establecido en las leyes y la normativa de protección de la infancia

así como la propia legislación de igualdad en relación con las políticas públicas dirigidas a las familias hay que señalar

de hacer un esfuerzo especial en la inversión económica en las familias con hijas e hijos con objeto de impulsar también las condiciones que

así como la emancipación de nuestros jóvenes en el ámbito económico y financiero esto significa mayor inversión en las políticas de apoyo a las familias

orientadas hacia un sistema universal o en otras medidas de apoyo indirecto a estas familias

además el impacto en las familias del envejecimiento de la población obliga a reforzar a las familias con personas mayores o en situación de dependencia o discapacidad

que reconozca y habilite el apoyo público a las familias monoparentales ya que la ley del parlamento vasco de trece barra dos mil ocho de apoyo a las familias adolece en este punto de una falta de desarrollo en el ámbito de las personas mayores y los servicios para la atención a la dependencia quisiera destacar tres cuestiones de nuestro informe

deben favorecer la participación de las personas mayores y reconocer su contribución a la transformación social otorgándoles el protagonismo y la capacidad de intervención

a las que se ha comprometido con esta finalidad el departamento de empleo y políticas sociales la estrategia de envejecimiento activo para euskadi

para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y promover su contribución al bienestar social en segundo lugar

presentado también en el dos mil dieciséis se argumentaba la necesidad de una reflexión en profundidad

así como el desarrollo normativo de los servicios contemplados en la cartera de prestación de servicios del sistema vasco de servicios sociales y la puesta en funcionamiento efectiva del mapa correspondiente por último en relación con las personas mayores quiero manifestar la necesidad

especialmente a través de la definición de una cartera de servicios y el desarrollo de un mayor número y variedad de recursos que permita dar respuesta tanto a las situaciones de dependencia sobrevenida como a las situaciones de dependencia transitoria

de larga evolución en cuanto a la igualdad hay que señalar que hemos tenido que lamentar algunos nuevos casos de violencia de género

con anterioridad el día veintiséis de enero alicia un bebé de diecisiete meses fue asesinada en vitoria

si bien en esto no encaja exactamente el concepto legal de violencia de género se trata sin duda de un infanticidio dirigido también contra la madre

y de sus autoridades públicas ante crímenes de este tipo y ante las agresiones sexuales en general denota una sensibilidad social creciente ante estos casos

de una sociedad vasca exenta en el futuro de violencia de género pese a los enormes e innegables avances que se han ido dando en materia de igualdad de mujeres y hombres lo cierto es que el dos mil dieciséis en euskadi como en el resto del mundo las mujeres se encuentran todavía en una situación de desventaja con respecto a los hombres especialmente en el ámbito laboral

la feminización de la pobreza la terca subsistencia de estereotipos

las dificultades en el acceso a la justicia todo ello justifica sobradamente la exigencia de que los poderes públicos se impliquen activamente en alcanzar este objetivo de igualdad

en la estructura económica y social de la perspectiva de género en euskadi subsisten también dificultades para la plena

y o visibilidad de las mujeres en el ámbito del ocio la cultura las fiestas el arte y el deporte se trata de ámbitos en los que sigue

una mayor presencia y visibilidad de las mujeres espetxeratuena da gure gizarteko talde ahulenetako bat

sortuz es preciso subrayar que la aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna en cumplimiento a lo expuesto en la disposición transitoria cuarta de la ley

es a los ojos del ararteko una medida favorable que sin duda ha contribuido durante el año dos mil dieciséis al bienestar de muchas familias en grave riesgo de exclusión residencial

esta institución ha insistido a la largo del pasado año en solicitar a las administraciones públicas vascas

a los retos establecidos en esta ley y para atender a las demandas de los arrendatarios públicos que con el transcurso del tiempo

dada la vinculación legal de la antigüedad en la inscripción del registro de los solicitantes de vivienda protegida

y al disfrute de determinadas prestaciones económicas el ararteko realizará el seguimiento oportuno del compromiso adoptado por el gobierno vasco según el cual a partir de este año

se practicarán de forma individualizada y con pleno respeto de las garantías formales

es una garantía para la protección de las personas y los grupos más vulnerables y una herramienta imprescindible para

en cuanto a seguridad ciudadana es preciso resaltar que la función policial es una de las más importantes en cualquier sociedad democrática

velando por la seguridad y la tranquilidad ciudadana y combatiendo la delincuencia queremos en consecuencia recalcar y agradecer la labor que realizan

las quejas tramitadas este año han vuelto a plantear cuestiones recurrentes

la investigación interna de las actuaciones supuestamente incorrectas

y su control interno y el control de los atestados y las denuncias administrativas en cuanto a los hechos que los motivan también han planteado cuestiones

las identificaciones en la vía pública y las intervenciones policiales con personas que sufren enfermedades mentales en la

del año pasado nos referimos a todas estas situaciones tenemos muchas quejas relativas a las sanciones de tráfico

hay que insistir que los informes policiales sobre accidentes de tráfico tienen que indicar fehacientemente si los agentes presenciaron o no el accidente

detallar los elementos que los agentes toman en cuenta para formularla y explicar por qué esos elementos conducen a la valoración

puedan conocer con la mayor exactitud posible lo sucedido y la motivación de las hipótesis que los agentes

en demasiados casos estos requerimientos ingurumenari buruz arartekoak etengabe adierazi die euskal

quejas en los ámbitos policial judicial y sanitario debemos dar cuenta de la mejoría observada en su gestión por parte de los poderes públicos

y se han adoptado nuevas herramientas de planificación que incorpora alguno de los criterios

atención en euskera por parte de la administración del estado sigue siendo motivo de quejas y resulta insuficiente el grado de cumplimiento de las medidas que han venido recomendando el comité europeo de las lenguas

y también el ararteko de entre las quejas presentadas en materia de deporte la mayor parte se han referido a las políticas públicas de promoción

practicadas por menores la información recabada para su resolución permite apuntar tres ámbitos de mejora las colonias

facilita a los padres y madres sobre situaciones de enfermedad o inadaptación en relación con el deporte practicado en edades previas al deporte escolar

dos barra dos mil dieciséis en la cual el ararteko reclamó a los ayuntamientos que garantizaran que las actividades deportivas organizadas en sus municipios para niñas y niños y en particular

estuvieran basadas en criterios educativos participativos y no competitivos el ararteko ha puesto de relieve finalmente los problemas para inscribir en el deporte federado a niños y niñas menores nacidos en otros países

tanto en la comisión de derechos humanos como aquí hemos tenido el placer de atender al ararteko

con gran atención en una sociedad perfecta y en unas administraciones perfectas no había necesidad ninguna de tener un ararteko uno se pregunta para qué está el ararteko para qué pues el ararteko primero es una confesión que

enorgullece no es que nos orgullezca pero que nos honra a todos de saber que las administraciones las cosas humanas no son perfectas

alguien tiene que velar por una mejor perfección y el ararteko para eso está para velar para que las administraciones se mantengan en el de la mayor corrección dentro de sus actuaciones yo creo que esta presentación del ararteko debiera preocupar sobre todo al gobierno porque aunque todos estemos orgullosos de tener un ararteko y de ver lo bien que funciona

y ver lo bien representados que estamos en reuniones internacionales en realidad

es dar tirones de orejas a los gobiernos y por tanto son los gobiernos los que tienen que estar verdadera verdaderamente preocupados

y por los datos que tenemos pues sí yo creo que los gobiernos particularmente el gobierno vasco tiene que estar preocupado porque miren primero han subido

tenemos aquí los datos tenemos

consultas al ararteko eso supone que cada día incluidos dividimos entre trescientos sesenta y cinco lógicamente los días laborales son menos cogiendo todos los días del año quiere decir que veintidós o veintitrés ciudadanos se acercan al ararteko para presentar una queja eso nos debiera preocupar a todos y en especial como digo al gobierno vasco porque esas ocho mil y pico consultas

son tirones de orejas y vamos a ver ahí podíamos plantearnos una posibilidad bueno

no tiene razón todo le parece una agresión y está injustificado bueno pues para ver si eso es cierto

muchas la primera que voy a citar es el área de medio ambiente que es la que sale mejor parada en el área de medio ambiente

de las consultas que se hicieron el ararteko

que la actuación había sido incorrecta en veintidós casos y no incorrecta en diez

el ararteko nos dice que la actuación había sido incorrecta en dos

en ocho pero es que luego vamos al resto de las áreas y podemos comprobar no se queja por quejar porque por ejemplo en justicia el ararteko nos dice que la actuación

ha sido en doce veces y la actuación correcta

aquí vemos que está tratando de trece actuaciones luego no podemos decir

no tiene razón no sí tiene razón claro ya si vamos a

de las quejas que recibe y que analiza el ararteko acaba fallando que incorrectas han sido treinta y uno

es decir cogemos cincuenta y dos quejas vamos a ver si la gente se queja por quejar pues no porque el mismo ararteko

que bastante más de la mitad treinta y uno ha habido una actuación incorrecta de la administración y a nosotros esto sí que nos preocupa que tenemos un ararteko

que es el gobierno el que pasa un examen cada vez

este es el examen al gobierno mucho más allá

no no es una institución la que examina al gobierno y la verdad yo siento decir pero el gobierno no sale bien parado no sale bien parado vamos a ver el ararteko

de dos maneras una falla sugiriendo cosas y esto son fallos de menor importancia porque

es que las cosas se podrían hacer mejor pero luego falla de otra forma

con las recomendaciones y estas sí que son importantes porque cuándo recomienda algo cuando ha habido una conculcación del ordenamiento

irregularidad cuando ha habido una omisión grave o cuando se ve forzado a hacer un recordatorio de legalidad es decir

el ararteko falla una recomendación señores estamos en problemas porque nos está hablando de que hay

irregularidades omisiones graves recordatorios de legalidad y saben lo que hacemos con esas recomendaciones

que son graves pues vamos a ir a todo lo referido al área de inclusión social

que él hace bueno de esas recomendaciones se aceptan dos y se actúa en consecuencia

se rechazan trece recomendaciones del ararteko que nos está hablando de conculcación del ordenamiento de irregulares de omisiones graves y nos recuerda la legalidad vigente bueno estoy hablando en plural pero no debiera

al gobierno porque son ellos es el gobierno el partido nacionalista vasco y el partido socialista los sujetos

de estos rechazos de recomendaciones

en osakidetza dos recomendaciones no se aceptan

una recomendación en salud tres recomendaciones y una sugerencia y luego tenemos las pendientes hay algunas que sencillamente

rebotan no las contesta entonces señores

este es su examen ustedes han sido examinados hemos visto como los que van al ararteko en

que sus quejas están fundamentadas y están fundamentadas en una actuación

pero a mí lo que más me preocupa es que ustedes rechacen recomendaciones si una recomendación es una advertencia de legalidad y es

lógicamente al ciudadano no le queda más remedio que ir a juicio y eso por su parte es una crueldad un ciudadano a quien el ararteko ya le ha dicho

no correcta por su parte y además una actuación que ha vulnerado la legalidad ustedes lo mandan a luchar no como david contra goliat porque david por lo menos tenía una honda sino como pues no sé un mosquito contra un elefante dinero tiempo etcétera etcétera

para que los ciudadanos no tengan que ir a juicio y ustedes con estas cifras porque

o a la frustración al rencor hacia a la administración hacia el enfado a muchísimos ciudadanos a muchísimos ciudadanos

los grupos políticos desde luego nuestro grupo político lo va a hacer les va a pedir explicaciones de por qué

no aceptan las recomendaciones del ararteko ya no me refiero a las sugerencias porque las sugerencias al fin y al cabo pues es una mejor forma de hacer y yo comprendo que la complejidad de los departamentos pues a lo mejor no permiten

ese excelente hacer pues porque los departamentos son complejos

por qué rechazan ustedes advertencias de legalidad eso es lo que francamente

me tiene no lo entiendo

ustedes han rechazado trece recomendaciones qué va a pasar con esas personas que además son las personas

que esas personas no tienen capacidad de ir a juicio es que no es entendible entonces termino aquí ya mi intervención

esto es un examen al gobierno el gobierno podemos ver la botella medio llena o medio vacía pero nuestra obligación es saber que la botella tiene que estar llena siempre y esta botella

muchos fallos tiene muchos agujeros por las que se le escapa el líquido y ustedes están rechazando

advertencias de legalidad y eso es gravísimo es cierto que no es como una advertencia de legalidad que nos pudieran hacer los servicios jurídicos de la cámara porque eso además tendría un nombre dentro del ámbito penal que es la prevaricación

el ararteko sigue siendo un árbitro un árbitro y un enlace entre los ciudadanos y sus gobiernos y les está diciendo a ustedes

están actuando conforme a derecho y ustedes lo único que hacen es o rechazar o ignorar creo que nos deben una explicación muchas gracias

señora presidenta consejero consejeras señorías buenos días a todos y a todas el futuro no debe ser una prórroga de nuestro presente y para que no lo fuera debemos

que nos fijemos eso exige un esfuerzo de anticipación experiencias propias y ajenas que nos sirvan de ayuda porque indagando en otros presentes

en ese punto de convergencia han estado están y estarán en nuestra opinión las funciones del ararteko entre la situación social de las personas y las responsabilidades que ejercen en nuestros días la situación social de las personas que no descubre

ocupan la sociedad y las circunstancias desiguales e injustas perjudiciales o discriminatorias

la falta de oportunidades laborales los condicionamientos culturales la ausencia de goce de derechos de acceso tanto al sistema de salud

a los servicios sociales al medio de transporte a la jubilación

efectivo sostenido y sustentable de sus derechos humanos sin discriminación o exclusión alguna

es verdad que hay nuevos retos pero también es verdad que la institución del ararteko con generosidad se ha ido adaptando y debe seguir haciéndolo a las nuevas exigencias de la sociedad vasca el trabajo que ha desarrollado en sus distintas intervenciones no solo en la ordinaria del dos mil dieciséis sino en los distintos informes extraordinarios que ya conocen

con respecto a los derechos humanos es imprescindible para situar a la ciudadanía vasca en los estándares de decencia democrática que queremos alcanzar

inquebrantable con derechos humanos fundamentales como la vida la libertad y la dignidad

hasta los llamados derechos económicos sociales y culturales o los de tercera generación

en un país muy cercano hay unas elecciones en las que se ha pedido el voto para vulnerando los convenios de derechos humanos priorizar la seguridad

la vamos a seguir reclamando porque lo que tenemos claro los y las socialistas vascas es que no hay civilización sin derechos humanos ni aquí ni tampoco en el reino unido

no puedo olvidarme también la labor que tiene el ararteko como agente de convivencia en nuestro país y lo explicaré tenemos unos retos

ante la ciudadanía vasca que impone la multiculturalidad y yo creo que sus actuaciones pueden contribuir a que esos derechos fundamentales sean algo más que un mero documento

en el discurso político creo que puede ayudar a la secretaría de derechos humanos a la comisión de derechos humanos y al propio gobierno y parlamento en esta labor porque el ararteko y aquellos otros que les han precedido en las funciones directamente encomendadas y en otras que han ido asumiendo ponerse en la situación de esas personas más desfavorecidas más excluidas y que han sufrido en carne propia la desigualdad

y en estos estertores de la crisis que todavía no han sido superados por esas personas

que deberá reinventarse y deberá seguir asumiendo esa labor

porque para nosotros esa labor es un signo de decencia democrática y lo hace ir más allá de ser un instrumento de participación

de las instituciones de confianza en la ciudadanía en esas instituciones y de vuelvo a repetirlo

en favor de los derechos humanos que como he dicho tienen distintos aspectos dentro de esa defensa de los derechos humanos y su labor en la ciudadanía vasca

en nombre del grupo socialista que es su colaboración e intervención

que ante la desigualdad no se hagan exitosos los discursos de exclusión

que generen una ansia de integración de esa nueva ciudadanía en lo que es la sociedad vasca yo creo que esa es la labor del ararteko

de poder garantizar que ese acceso a los servicios públicos en igualdad y en condiciones de excelencia se haga por todas las personas en igualdad

en el futuro personalmente además creo que tanto él como

compañeros y compañeras suyas en otras comunidades autónomas

internacionales me ha parecido sugerente siempre destacar el perfil de un colaborador crítico de la autoridad sin complacencia y son rebeldía innovadora para la visión superadoras de las dificultades claro que hace recomendaciones

es que si no estaría también ejerciendo una labor no

le requerimos pero además de esas recomendaciones el que haga como un agente defensor de los derechos humanos defensor de la lucha contra las discriminaciones y defensor de mantener a la ciudadanía vasca en unos estándares democráticos decentes nos parece fundamental

al informe en concreto que he destacado alguna de las cuestiones porque ni tenemos los cuarenta y cinco minutos que ha dispuesto el ararteko ni creo que las demás personas

los parlamentarios a los que no vemos afectados en este debate sino por los demás es cierto que se produce un incremento del número de actuaciones de la institución un setenta por ciento del dos mil diez y el dos mil dieciséis de las intervenciones pasando además

en el dos mil dieciséis eso viene a poner de manifiesto nuevamente el enorme predicamento que la institución

continuo y serio a lo largo de estos treinta años de experiencia

económica pero también de valores los y las ciudadanas se han dirigido a la

en busca de ayuda interlocución y soluciones es más analizando las propias cifras aportadas en las que vemos que solo un cincuenta por ciento se deben a una mala

los y las ciudadanas buscan el ser oídas y recibidas por las administraciones hecho que no siempre se da en ocasiones todavía creemos que demasiadas la respuesta por parte de las distintas administraciones compelidas

de actuación pública todavía un poco prepotente y distante con el servicio o ciudadano que creo que todas y todos pretendemos

que la mayoría de las quejas se sitúan y van hacia el área de la defensa

vasco de servicios sociales relacionado con las diferentes áreas desde la inclusión social la inmigración enfermedad mental infancia mayores dentro de este ámbito

a señalar de forma exponencial aquellos expedientes que tienen que ver

de lanbide pero también es cierto que hay un informe del ararteko al respecto

que hemos empezado a trabajar en el gobierno y en el parlamento vasco destacando la disposición no solo del gobierno sino de todas las fuerzas parlamentarias en esa responsabilidad

a todas de poner los consensos y el diálogo necesario

respuesta a la ciudadanía desde el grupo socialista mostramos nuestra disposición absoluta porque consideramos que se abre una oportunidad para que todas

que busquen el blindaje del sistema de protección social vasco uno de los mayores logros de nuestro autogobierno que debe garantizarse para las próximas décadas se ha presentado un diagnóstico se va a estudiar dentro de la ponencia y yo creo que por lo menos en este momento que es el punto de partida los esfuerzos deben

las posturas enfrentadas y a conseguir esos consensos necesarios con el objetivo de blindar ese sistema vasco de servicios sociales que nos

y dentro del estado también no puedo dejar de recordar un aspecto que a mí me parece fundamental respecto al informe del ararteko

y la adolescencia a la que agradezco además infinitamente sus aportaciones en particular quiero hacer visible dentro de todos

el ararteko y poner voz a uno de los peores atentados que no se produce un día sino todos los días por la sociedad democrática que es la violencia machista

decir algo más y hacer algo más también es poner en valor lo que hace cada institución y ponemos desde aquí en valor lo que ha hecho la institución del ararteko porque yo creo que precisamente parte de una cuestión que además

ancla sus pilares en la desigualdad y en la desigualdad

es donde podremos empezar a atender más y mejor a las mujeres y a los y las menores que se ven afectados por este déficit democrático no voy a citar las cifras porque no sé si

puede asumir las cifras de mujeres muertas y de menores

sin sonrojarse por no haber puesto en la prioridad y en la urgencia de las políticas activas afrontar ese debate pero diré que sí

lo haya situado en una de sus prioridades cuando realizan los trabajos de infancia y adolescencia esas son las cuestiones que nosotros queríamos

para que nos pongamos a trabajar en esas quejas centradas en los servicios sociales y en el acceso a los mismos creemos que también debemos de poner el acento acceso sea igualitario para todas las ciudadanas con independencia de cómo han pasado a formar parte de nuestra sociedad de donde vengan y cuándo hayan venido y queremos que el ararteko siga ayudando

y a los y las menores afectados por la violencia machista y por agresiones que tienen que ver también como las sexuales muy directamente

y otra vez en una desigualdad que tiene que afrontarse como prioridad de esta institución del gobierno vasco y de todos los gobiernos que entiendo se consideren

erakundea da y no parece ser solo en nuestra opinión sino en un sentir cada vez más sentido en la ciudadanía a la luz de los datos vemos como en el año dos mil nueve el ararteko realizó seis mil doscientos trece actuaciones que han ido aumentando progresivamente hasta llegar a las casi a los once mil del año dos mil dieciséis así

va creciendo legitimándose en su misión y cumpliendo sobradamente con su cometido principal de atender a la ciudadanía en relación a quejas demandas o consultas sobre la administración pública

pero no solo esto en dos mil dieciséis además han realizado un informe extraordinario de los servicios sociales que hemos podido abordar en comisión jornadas de las que se ha extraído material interesantísimo en materias como juventud o asilo

y todo esto dicho sea de paso con un presupuesto un once por ciento menor del que tenía la institución en el año dos mil nueve entendemos que esto ha tenido que suponer un esfuerzo y una sobre carga

ser comentada y agradecida públicamente zuen lana ezinbestekoa da además del agradecimiento entendemos que estos datos merecen un tirón de orejas a este parlamento porque si no nos preocupamos y no nos ocupamos de lo que es nuestra responsabilidad

en una mera oficina de recepción y trámite de quejas desde elkarrekin podemos vamos a trabajar siempre en defensa del ararteko y lo haremos porque entendemos que su papel es fundamental que es fundamental que nuestro ararteko siga siendo una institución proactiva en la

en su independencia en la defensa de los derechos humanos y para esto no hay duda hace falta dinero y dicho esto me quiero centrar en el contenido del informe entendiendo que una exposición de quince minutos hace difícil abordar todos los temas que toca vaya por delante una disculpa señor lezertua y a su equipo por las cosas

analizando este informe toca decir en primer lugar aquello que acogemos como principal preocupación y que es el hecho de que el treinta y seis coma cincuenta y nueve por ciento de las quejas recibidas sean sobre materias que corresponden al departamento de empleo y políticas sociales es una pena

setecientos cincuenta y nueve quejas señorías setecientos cincuenta y nueve corresponden a materias derivadas de las prestaciones económicas de la ley de garantía de ingresos y la inclusión social

para que en la propuesta de mejora de la normativa del gobierno se recojan solo algunas y con matices

preocupante porque en opinión de elkarrekin podemos resolver los casos individualmente no es una solución sino un parche o nos ponemos serias con las cuestiones que tienen que ver con la gestión de lanbide o estas malas prácticas denunciadas por los colectivos sociales y que encuentran un respaldo en las quejas y recomendaciones del ararteko seguirán produciéndose preocupante porque las propuestas de mejora no van a arreglar setecientos cincuenta y nueve quejas

preocupante porque haciendo oídos sordos estamos poniendo en riesgo a una parte muy vulnerable de esta sociedad y eso no debemos permitirlo

este sistema es fundamental entiendo que como para el resto de grupos de esta cámara y siguiendo con este tema consideramos algunas cuestiones que merece la pena destacar sobre las resoluciones de denegación en materia de renta de garantía de ingresos algunos procedimientos y tiempos que se nombran en el informe

la ley como no puede ser de otra manera está para cumplirse más una ley que

una administración que se entienda responsable no puede ocultar información modificar la normativa a su antojo y crear de la nada criterios y sanciones que no se contemplan en la ley que es lo que extraemos de algunas de las cuestiones contenidas en este informe

en la que dice que lanbide hace una interpretación extensiva de las previsiones normativas

no parecen tener nada que decir en algo tan central en sus vidas como el sustento que reciben en este sentido queremos también destacar las denuncias que se hacen sobre el trato a trabajadoras autónomas a familias monomarentales a personas con discapacidad a personas migrantes apátridas refugiadas

a lo que no toca hoy nos parece esencialmente grave lo que tiene que ver con los efectos dramáticos que sobre las vidas de las personas tiene el hecho de que lanbide no respete de la forma escrupulosa que se le presupone los procedimientos administrativos y esto no me lo estoy inventando si lo leen con cautela es una parte importante de lo que recoge el informe del ararteko recogemos con interés lo que nos plantea sobre la tensión existente entre el empuje para lograr la activación laboral

así como la llamada de atención que viene a decir que las personas en situación de exclusión grave

esto nos preocupa porque con propuestas como las presentadas el treinta y uno de mayo estas situaciones se pueden agravar aún más y el contrasentido que manifiesta el ararteko en su informe se haría insalvable

que están pidiendo ayuda y atención que se están quedando fuera en este sentido también consideramos que estamos en un tiempo de oportunidad para recoger las recomendaciones más que sensatas imprescindibles que se pueden extraer de este gran trabajo que ha realizado el ararteko para construir un sistema de garantía de ingresos

porque y aprovecho esta tribuna para responder es una pena que se haya marchado el señor lehendakari que

no es suficiente para una vida digna para nosotras eso es sentido común nuestros mayores con pensiones mínimas las familias monomarentales no pueden ser rehenes de sus pactos

antes que a organizaciones y movimientos sociales nosotras sin extremismos vamos a promover una defensa férrea del derecho a una vida digna de quienes peor lo pasan

es poner parches espero poder trabajar para que esto cambie sinceramente y esperamos hacerlo sin duda con espacio imprescindible para el ararteko en esto

nos preocupa y mucho el hecho de que no se tengan en cuenta recomendaciones que se suponen aceptadas o que estas no se apliquen a pesar de lo dicho

esto es preocupante pero sobre todo una irresponsabilidad que hay que atajar inmediatamente

por la impecabilidad de la administración pública diga cosas y se mire para otro lado un ejemplo de esto y una cuestión que tenemos que decir aquí alto y claro

del menor en las políticas públicas y también concretamente en el sistema de garantía de ingresos una recomendación que sabemos viene desde el año dos mil quince

sin aplicarse en esta recomendación se establecen directrices claras sobre cómo incorporar el cumplimiento de obligaciones que establece el comité de los derechos de los niños así como una normativa

a lo que cabría esperar lanbide plantea que si como consecuencia de suspensiones o extinciones de la prestación

en esto se equivocan se equivocan porque lo dice la legislación de infancia se equivocan tal y como lo responde la diputación vemos como lanbide está echando un balón fuera y ese balón

menos mal en esta recomendación repito por si no les ha quedado claro es del año dos mil quince y sigue sin aceptarse

otros derechos que se están viendo vulnerados porque las exigencias procesales no se están conjugando con el celo que debieran con los criterios de protección a la infancia

en que haya espacios amables tanto en justicia como en seguridad para menores de edad especialmente

específicos así como el hecho de que no se esté atendiendo aprevenir la victimización secundara

coincidimos con el ararteko en que la lectura de las actuales políticas de justicia toman al menor en consideración

a la prevención como una premisa y al menor como una víctima que por lo general es un paso previo a lo que viene después

con la igualdad y como ha dicho el ararteko a pesar de los

en euskadi como en el resto del mundo sigue habiendo trabajo por hacer en elkarrekin podemos esto es una cuestión central nos preocupa

estemos desatendiendo algo crucial lo vemos en recomendaciones como las que tienen que ver

de violencia machista que manifiestan sentirse en desamparo no podemos permitir que quien huye de algo como la violencia machista quede desamparada

en la realidad pasando a otra materia como la educación vemos fundamentales quejas que tienen que ver con problemas de gestión nosotras insistimos no se trata

prioridad y por lo tanto entendemos que es fundamental garantizar la participación de esa ciudadanía no solo en educación ya que el ararteko ha manifestado

trabajemos con las personas para que ellas nos digan cuáles son normas y procedimientos que no funcionan escuchémoslas y ayudemos a hacer nuestra administración un espacio mejor para todas aprovechando esto quería también mencionar algo que nos preocupa en materia de política lingüística

entre unos ayuntamientos y otros al aprendizaje del idioma consideramos que el gobierno vasco tiene un papel preeminente en la defensa y promoción del euskera como un bien de todas euskara

y para ir aligerando que se me acaba el tiempo solo un par de apuntes en este informe vemos un aumento o mantenimiento de quejas y reclamaciones que tienen que ver con el no acceso a derechos fundamentales y entendemos que esto nos merece una atención preferente

que entendemos compartida con el ararteko las dificultades de acceso a los servicios sociales al derecho a la vivienda al derecho a la salud en concreto en materia de vivienda

por las consecuencias que estas cosas pueden tener sobre el acceso real al derecho subjetivo de la ciudadanía vasca en relación al acceso a la salud

al sistema de las personas extranjeras pero también de las personas más vulnerables en situación de exclusión social dificultades que entendemos hay que atajar de inmediato y como una prioridad

porque consideramos que el trabajo realizado por el ararteko y su equipo es impecable consideramos también que nos da materia más que suficiente para reforzar y enfocar la dirección de nuestro trabajo porque es una muestra de dónde están las dificultades y preocupaciones de la ciudadanía entendemos también que este informe da muchísimas pistas y muchísimas campos de trabajo sobre todo al gobierno a la administración pública

impecables eficientes y eficaces en el desempeño de su trabajo creo que tenemos el reto

tratemos de coger el guante que hoy nos lanza el señor lezertua tratemos de cuidar a nuestro ararteko y a su excelente trabajo y lo más importante vayamos a hacerle caso y blindemos así los derechos de la ciudadanía la mano de elkarrekin podemos está tendida para trabajar y mejorar en todos aquellos aspectos
en los que hemos detectado fallos mila esker besterik gabe eskerrik asko

adingabeen interes nagusia herri administrazio guztietara zabaltzea y muchas veces las desigualdades no existen solo en el ámbito económico o en la cobertura de las necesidades básicas también existen carencias en ámbitos tan concretos e ilógicos a nuestro entender como en la actuación en la atención a la diversidad afectivo sexual y de género en el ámbito educativo ahí una referencia clara a la falta de material didáctico e incluso

para atender correctamente y con criterio estas situaciones bestetik arartekoak udal gizarte zerbitzuen egoerari buruzko txosten berezia ere

y a pesar de esas partidas económicas destinadas a subvenciones

o a las ayudas de emergencia social sin duda es un tema que a nuestro entender deberíamos de resolver cuanto antes y repetiremos

son muchas las cuestiones las quejas las situaciones graves recurrentes que se repiten año a año en el ámbito de la inclusión social y en muchos otros tenemos la sensación de que dentro de un año volveremos a denunciar exactamente las mismas situaciones beste aldetik etxebizitzaren inguruan

ez da konpondu por otra parte en cuanto al departamento que más quejas ha recibido se encuentra al igual que en años anteriores el departamento de seguridad

que mejor valoradas están por la ciudadanía los problemas más frecuentes continúan siendo y eso no se termina de corregir la demora en proporcionar la información la falta

de la documentación que se solicita durante la reunión de la comisión hace unos días el ararteko compartió la preocupación de este grupo en cuanto a los problemas que se han detectado en los sistemas de videograbación en los centros de la ertzaintza que han podido visitar

no cumpla las condiciones que a su juicio tiene que poseer este mecanismo para ser eficaz

dentro del recinto de la comisaría entre otras cuestiones por tanto en general no se han incorporado de nuevo propuestas sobre

del año dos mil once hace ya seis años otro ejemplo más del incumplimiento reiterado de muchas de las recomendaciones que el ararteko hace

inhumana e insostenible y como él por desgracia son muchos los presos y las presas vascas

aun estando gravemente enfermos y enfermas y hablando de enfermos y enfermas aunque desde otro ámbito desde sus casas en este caso en el área de la salud nos encontramos en este informe del ararteko con diferentes preocupaciones que han sido y son objeto de trabajo de este grupo parlamentario

extranjeras sobre todo en el caso de los menores consecuencia del real decreto ley dieciséis barra dos mil doce también son motivo de preocupación y queja como la de este grupo las listas de espera y tantos otros asuntos que por falta de tiempo no podemos detallar

para este grupo el hecho de compartir esas preocupaciones y esas propuestas con el ararteko y que contrasta con la soledad parlamentaria en las que nos solemos encontrar